el gobierno vasco en su programa de gobierno hace pivotar todas sus políticas públicas sobre un eje principal el compromiso con las personas

entre otros en el ámbito de la salud de los servicios sociales y de forma muy visible en el ámbito de la educación

también se refleja en un ámbito muy concreto y fundamental para el sistema educativo vasco me refiero a la garantía de universalidad en el acceso a las enseñanzas bajo los principios de igualdad y equidad

la garantía de universalidad en el acceso a las enseñanzas guarda una relación directa con la política de ayudas y becas para el estudio de la escolarización

consideramos que esas ayudas son una pieza fundamental para remover los obstáculos de naturaleza socioeconómica que pudieran incidir en el libre acceso a la enseñanza no universitaria por eso

para que en euskadi modifiquemos dichas becas en ese sentido le formulo la siguiente pregunta

como digo nuestras becas han sido recurridas por el estado por primera vez

y como es lógico nos vemos obligados a defender nuestras competencias no solo en este caso sino ante otros requerimientos como el realizado o los realizados a las ope

he de destacar que aún con una situación económica difícil como la que hemos vivido

que entendemos imprescindibles no hemos dudado en dedicar las cuantías económicas necesarias a garantizar la igualdad de todo nuestro alumnado en el acceso a una educación de calidad

que ha pasado de cincuenta coma dos millónes en el dos mil doce a cincuenta y cuatro coma tres en el curso dos mil catorce dos mil quince esto es cuatro coma uno millónes más

en su caso se incrementará para responder a todas las necesidades que en este ámbito pudieran plantearse este dato traducido al número de alumnado becado

destaca el número de becas destinadas a material didáctico que asciende a ciento veintitrés mil setecientos dos y el de las destinadas a comedores

que el treinta y cuatro coma veintiséis por ciento de alumnos y alumnas de nuestro sistema educativo reciben ayudas para aspectos relacionados con la escolarización

sinestearekin batera sistema hori irmotasunez defenditzera eramaten gaitu nuestro sistema de ayudas diseñado en el marco de nuestro específico ámbito competencial

en el que todos nuestros niños y niñas tienen garantizado el acceso a la educación en igualdad de condiciones eskerrik asko

que nos acaba de dar sobre los requerimientos del gobierno estatal en materia de becas en ese sentido queremos denunciar

de becas propio como usted ha dicho se trata de una competencia transferida que gestionamos en base a los intereses de la sociedad vasca y de nuestra realidad más cercana españa recurre el sistema vasco de becas por el mero hecho de ser diferente lo que no reconoce es que nuestras becas son más equitativas y más garantistas

estamos ante un intento más de centralizar todo lo relacionado con la educación y en ese sentido nuestro grupo parlamentario y el partido nacionalista vasco se opondrá

estrategia integral bat tiene el gobierno vasco una estrategia integral para garantizar la actividad y el empleo
en la planta que la multinacional arcelor tiene en zumarraga eskerrik asko casanova jauna erantzuteko

gure funtzionamendua legealdi hasieratik si vamos a la empresa arcelormittal se trata de una

no en estos últimos momentos solamente a la que hemos prestado especial atención desde el inicio y no hay más que ver que en septiembre de dos mil trece ya estábamos hablando del problema que suponía los precios de la energía para este tipo de industria

pero más allá nos encontramos con el problema de china que nos hace un dumping específico y sobre todo a la baja demanda como consecuencia de la crisis del producto que se desarrolla en zumarraga por tanto es un caso especial problemas generales es decir problemas mundiales

problemas de energía que se están tratando en madrid y problemas específicos en euskadi desde donde también podemos trabajar por tanto la propuesta que se he presentado desde el gobierno analiza los tres ámbitos el problema

a tratar en europa donde ya estamos trabajando el problema de la energía en madrid donde también estamos trabajando y los problemas que podemos atajar desde euskadi o desde donde vamos a empezar a trabajar una propuesta presentada al comité de empresa y a los ayuntamientos por cierto y a la diputación foral de gipuzkoa de todos los colores ayuntamientos del partido socialista

de eaj pnv y con el comité de empresa donde el pasado lunes se obtuvo un acuerdo unánime de tenerlo como documento base para empezar a trabajar con la empresa y ayer tras la reunión del comité de empresa con la empresa

el propio comité afirmó que era un plan que podía garantizar la continuidad de la empresa y que confiaban en el trabajo que pudiéramos hacer de forma conjunta pero desde luego para ello necesitamos dos cosas la implicación de la empresa

los trabajadores están implicados y están trabajando ahora nos toca a nosotros como gobierno y como empresa trabajar e implicarnos para que esto sea una realidad eskerrik asko eskerrik asko

en el sector del acero tiene impacto el dumping pero no es lo que tiene relación directa

está improvisando yo les deseo suerte porque lo que está en juego es el futuro de seiscientos personas

que es más importante que nuestras disputas partidistas como es la salvación de esos seiscientos puestos de trabajo

repito ustedes están improvisando y la mejor prueba de ello es que presentaron un plan de forma precipitada

en la que se contemplaba realizar incluso inversiones que ya están hechas

obsolescencia parcial porque no se ha invertido en renovación y diversificación del producto ni en la formación de trabajadores y trabajadoras el gobierno vasco sabía desde hace meses de la problemática

en este tema como en otros van a remolque de los acontecimientos tratan de apagar los incendios en lugar de prevenirlos

todo el mundo menos al parecer el gobierno vasco que espera que estalle la crisis para ponerse a correr

ante las crisis este país necesita un gobierno proactivo y no reactivo que escaneé permanentemente los sectores industriales y detecte los problemas

el gobierno sabe que hay sectores en crisis como el acero oil gas no esperen al próximo cierre

si pone encima de la mesa una propuesta plausible de viabilidad al contrario

pero la empresa necesita algo más que buenas palabras cualquier plan debe no solo evitar el cierre a corto plazo sino garantizar la viabilidad a futuro para ello serán necesarios recursos presupuestarios de qué partida se dispone para ello en este sentido nuestro grupo ha presentado públicamente una propuesta para la creación de un fondo de apoyo a la industria que entre otras cosas generaría dotación suficiente para atender a las necesidades de financiación y capital de empresas en crisis como zumarraga y acb estamos contrastando esta propuesta con agentes sociales

al igual que hemos hecho con la propuesta para suscribir un gran pacto social para alcanzar el tres por ciento de la inversión

en cinco años del tres por ciento del producto interior bruto estando todo el día en el teleberri se pueden ganar elecciones no lo dudo pero no se saca adelante el tejido industrial de este país este país necesita una política industrial real los sindicatos ya han estallado ante la política de puro marketing de su gobierno por eso los sindicatos mayoritarios del país han convocado una manifestación

me alegro porque el comité así lo ha decidido en primer lugar la propuesta

porque considera todo hemos introducido nosotros mismos unas cuantas inversiones más que consideramos importantes

atacábamos desde el principio la obsolescencia la diversificación las inversiones y la formación estaban en el documento inicial pero no me voy a poner a discutir eso el plan de viabilidad lo ha de realizar la empresa nosotros somos colaboradores y lo vamos a ser desde el principio hasta el final

siga vigente que tenga un plan industrial y que tenga un plan industrial a futuro

de nuevo producto y de ataque a problemas estructurales en general del acero y a los que

analice usted bien la propuesta que no es sino una propuesta para trabajar con la empresa

legebiltzarkideok egun on denoi en su balance de estos mil y pico días de gobierno

de los principios que recoge su código ético código ético heredero del que inició estableció por primera vez el lehendakari patxi lópez así que desde el grupo socialista solo podemos aplaudir

así como toda sociedad o empresa pública respondan a criterios de imparcialidad objetividad en la toma de decisiones

por la honestidad y el desinterés subjetivo usted asumió esta guía de comportamiento pero también heredó y asumió la personación

que según los indicios que contempla hoy la justicia pudieron cometer delitos de prevaricación tráfico de influencias malversación de fondos públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios ahora el gobierno que usted preside debe tomar una decisión que esperamos responda

debe decidir si presenta acusación contra aquellas personas que en el pasado desde la gestión del servicio público de salud y según deducen los tribunales pudieron aprovecharse para beneficio propio de los recursos de todo y es importante saber cuál es esta decisión

que se debían mejorar en el futuro los procedimientos de contratación como ya se ha hecho y que estimó oportuno además poner en comunicación

y las investigaciones realizadas en esta comisión de investigación y esto se hizo en contra del grupo mayoritario de la cámara que era el suyo el grupo parlamentario del pnv y en medio de graves acusaciones por parte de quien hoy es su consejero

del dos mil once además de insultar a los trabajos de la cámara defendió la limpieza de gestión que hoy cuestionan los tribunales por ello le apelamos

y a su responsabilidad que es la defensa como lehendakari de los intereses de todos los ciudadanos de todos los vascos no solo de los afiliados a su partido

para que cada parte personada en este caso el gobierno vasco a quien apelamos aquí actúe en el auto judicial y le preguntamos de qué manera
va a depurar cuantas responsabilidades se puedan derivar de este caso eskerrik asko roncal anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

sailburuok jaun andreok egun on señora roncal vamos a la cuestión vamos a la cuestión de la pregunta vamos a dejarnos

el código ético el origen de la historia político institucional

bien mire la posición que va a mantener el gobierno vasco es exactamente la misma que ha mantenido hasta la fecha la misma que se mantuvo en la anterior legislatura señora ronca el gobierno está personado en esta causa

el proceso judicial está abierto y en función de los requerimientos o cuestiones que se susciten el gobierno vasco se seguirá personando y actuando con total objetividad

gestión sumamente rigurosa de aquel equipo sanitario incluidos los hoy acusados

nauseabundas acusaciones de los grupos políticos que quisimos investigar los hechos falsedad de acusaciones son solo algunas frases de aquel documento que firmaba el hoy consejero señor darpón como también decía ese documento

y esos caminos de la política han llevado que a quien criticó al gobierno por los hechos que están hoy en los tribunales

frente a quienes la justicia considera hoy que pudieron haber delinquido y

es esa tortuosa política cuando alguien se equivoca y no dice que efectivamente se equivocó y reconoce la equivocación y es que ese caso además han realizado insultos contra esta institución contra esta propia cámara es por eso por lo que le exigimos y le pedimos que muestre una actitud enérgica

eskerrik asko legebiltzarburu andrea habla usted de contradicción señora roncal mire el gobierno

y es mantener su personación en la causa como acusación particular precisamente para defender el bien general por encima siempre de cualquier opinión personal y quiero recordarle además que todos los directores económicos del gobierno vasco todos los directores económicos del gobierno vasco incluidos

los del gobierno lópez han afirmado que no se pudo producir perjuicio económico determinado para el gobierno todos los directores económicos señora roncal dado que los servicios contratados se realizaron en los términos convenidos

no son palabras mías señora roncal son las declaraciones de los propios directores durante la instrucción del caso y en cuanto al manifiesto que cita señora roncal le aseguro taxativamente ya que esto es lo que me exige le aseguro taxativamente que no existe ningún conflicto de intereses entre una opinión personal y la defensa del bien general

fue hecho público durante los trabajos de la comisión de investigación hace ahora cinco años y lo que hacía ese manifiesto era criticar

interesadas que se produjeron de sus contenidos

contraria a la normativa aprobada por la propia comisión y por lo tanto sujeta a crítica beraz roncal andrea gai hau epaitegian dago

el fraude destapado en las adjudicaciones del servicio de comedores escolares de la escuela pública que

millónes de euros tiene su origen en el propio sistema de contratación que estableció el gobierno vasco los técnicos que supervisaban el proyecto

sabían que fueron siempre que eran las mismas empresas las mismas siete empresas las adjudicatarias de toda la contrata lo conocían

también lo conocían pero se dejó hacer no se revisó no se tomaron medidas y esto nos lleva a pensar que nada de este caso hubiese podido ocurrir sin algún tipo de connivencia activa o pasiva por parte de la administración por eso queremos señor urkullu que nos diga qué ha hecho desde que se conoció

señor oyarzabal me parece muy bien que quiera usted que sea el propio lehendakari quien le responde

con respecto a este tema lo que hace pensar que

ekintza la administración ha sido la principal perjudicada como ya se precisó en esta cámara en su investigación

no ha apreciado y lo dice taxativamente en su informe indicio alguno de connivencia o favorecimiento por parte de la administración en las conductas

y ha alcanzado un acuerdo con una amplia mayoría en relación al fraude de las empresas de catering de los comedores escolares eskerrik asko uriarte

supongo que ya no hace falta que digan nada ya lo han dicho todo nosotros queríamos escuchar al señor urkullu y el señor urkullu no responde a pesar de que

que el mayor fraude detectado en una contratación pública doscientos millónes de euros

las familias vascas las madres y padres que llevan a sus hijos a los comedores escolares y que pagan unas tarifas muy altas

al principio de esta legislatura ya había denuncias al principio de esta legislatura ya trajimos este caso aquí ya había un runrún de que algo no funcionaba en esa contratación todo se negó por parte de los responsables del departamento señor urkullu

hasta que la autoridad vasca de la competencia confirmó el fraude concertación de empresas sobreprecios sobrecostes quebranto a las arcas públicas ustedes no hicieron nada hasta que no trajimos aquí y salió esto a la luz pública a través de los medios de comunicación ustedes no se movieron ustedes actúan tarde señor urkullu por mucho que no quiera contestar

se ha perjudicado al conjunto de las familias vascas se ha beneficiado a determinadas empresas con contratos millónarios

concurrencia y usted lo sabe y por eso exigimos que se determine las responsabilidades este parlamento mandató al gobierno

ya ha ordenado que se acuda a la fiscalía para depurar responsabilidades si las hubiera penales pero nosotros creemos que hay que exigir responsabilidades políticas señor urkullu alguien tiene que asumir las responsabilidades políticas necesitamos

queremos saber si está dispuesto a respaldar una comisión de investigación en este parlamento queremos saber si usted está dispuesto si de verdad usted está dispuesto a llegar hasta el final

si ustedes pretenden que sigan las mismas empresas multadas por la autoridad vasca de la competencia beneficiándose de los mismos contratos y a precios a sobreprecios queremos saber si ustedes

los dieciocho lotes y además a los máximos precios usted maquilló un nuevo contrato los responsables

pero son las mismas empresas las que se llevan los mismos contratos a sobrecoste

no reclame el quebranto a las arcas públicas no reclame el dinero a esas empresas mientras usted

ese concurso que permite a los mismos que cometieron el fraude

mayor contrata del departamento de educación usted no va a tener credibilidad y desde luego usted se hace corresponsable de este fraude

en la que la principal perjudicada es esta administración sí esta administración toda la información detallada está disponible en la propia resolución y creo que ya en el debate

anteriormente en esta cámara quedó claramente patente cuál fue su participación en la legislatura anterior por lo tanto señor oyarzabal creo que

como ya he dicho este asunto además ha sido debatido en esta cámara el parlamento vasco ya se ha pronunciado al respecto y ha alcanzado un acuerdo con una amplia mayoría en relación al denominado fraude de las empresas de catering en los comedores escolares

y ha alcanzado un acuerdo con una amplia mayoría en relación al fraude

que votaron en contra el gobierno más allá de las medidas que ya ha adoptado que ya ha adoptado en el ámbito de la contratación pública del servicio de comedores escolares

es más este gobierno ha adquirido a través de su programa de gobierno el compromiso de un gobierno ejemplar

transparente responsable y rigurosa en la gestión de los recursos públicos le aseguro que este es un compromiso que tenemos plenamente interiorizado y que trabajamos día a día para su consecución

señor oyarzabal nosotros no tenemos ningún problema en acudir a este parlamento

el acuerdo pero en este caso yo creo que habiéndose tratado en varias ocasiones y adoptado un acuerdo por la propia cámara recientemente pudiera pensarse que se trata únicamente de desacreditar

y simplemente tener unos minutos más de publicidad y no se preocupe señor oyarzabal que hoy

sí gracias presidenta buenos días a todas y a todos señoras y señores consejeros señor lehendakari en una información publicada por un medio de comunicación

se titulaba el gobierno vasco corregirá el déficit de atención a los supervivientes de atentados la palabra

utilizado por los protagonistas de la rueda de prensa en la que se informó de diversas actuaciones relacionadas con los testimonios de víctimas del terrorismo por lo tanto el propio

que ha habido un déficit en la atención a esas víctimas nosotros estamos de acuerdo no solo ha habido un déficit de atención a estas víctimas supervivientes

a las víctimas del terrorismo ha habido un déficit histórico y en concreto y especialmente

de su mandato el asunto es cómo va a corregir este gobierno

histórico es decir qué medidas va a tomar en beneficio de las víctimas en la misma comparecencia de prensa los responsable de gogora y de la secretaría paz y convivencia cifraron en noventa y dos

familiares de asesinados por organizaciones terroristas que accedieron a grabar sus testimonios de un total de doscientos ochenta familias a las que se dirigieron solo

en esa iniciativa sin embargo se negaron a detallar cuántos de los testimonios pertenecen a familiares de ciudadanos asesinados por lo tanto aquí surgen algunas preguntas por qué solo residentes en euskadi

de doscientos ochenta familias a las que se dirigieron a qué piensa que es debido ello quizás falta de confianza gobierno por parte de las víctimas de eta a consecuencia de la actuación de este gobierno para con ellas

tienen ese dato y finalmente no es un poco tarde para que el gobierno

a los supervivientes de atentados terroristas por parte de este gobierno no es demasiado tarde en fin estas son las preguntas concretas que yo le quería plantear en esta

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro este gobierno vasco y los anteriores se han tomado en serio la cuestión de las víctimas todos los gobiernos

pero hay también realidades que permiten una valoración global positiva usted habla del déficit histórico no sé si el déficit es histórico desde solamente hace tres años a esta parte

por ser honestos también es necesario subrayar las realidades que permiten una valoración global positiva no es una actitud que hemos emprendido ahora señor maneiro en dos mil trece el instituto vasco de criminología realizó un estudio sobre necesidades y demandas de las víctimas

echaban en falta una atención más personalizada y deseaban tener una participación directa en los procesos sociales de construcción de la memoria con su testimonio en dos mil catorce

la dirección de víctimas del gobierno vasco se puso en contacto una por una con todas las familias residentes en euskadi de víctimas asesinadas por acciones terroristas estas entrevistas con cerca de trescientos familias permitieron

mejor sus necesidades y demandas y estamos hablando de antes de la creación del instituto gogora señor maneiro

los testimonios de cuantas familias de víctimas asesinadas quisieran hacerlo hoy tenemos ya el testimonio grabado de más de noventa víctimas

hemos puesto y ponemos en marcha la tercera fase para grabar los testimonios de personas heridas y personas amenazadas no nos conformamos señor maneiro hoy hemos enviado a este parlamento el informe sobre la injusticia padecida

por el instituto de derechos humanos pedro arrupe y no nos conformamos señor maneiro vamos a seguir actuando sabemos que tenemos mucho por hacer para lograr la auténtica convivencia

en política de víctimas y lo digo sinceramente siempre se puede dar un paso más eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

lehendakari efectivamente se han cometido errores por parte principalmente del nacionalismo vasco de su partido político y de su gobierno en relación a las víctimas de eta

insensible este es el error fundamental y yo se lo he recordado durante estos últimos años en innumerables ocasiones y usted me ha acusado por ello de hacer demagogia y resulta que usted después reconoce que efectivamente existe un déficit y que se han cometido errores y es lo que yo

tres años y medio en relación con su actitud para con las víctimas del terrorismo y evidentemente no nos conformamos y seguiremos haciéndolo pero cómo piensan

únicamente grabando testimonios nos parece evidentemente muy poca cosa yo creo que estas víctimas merecen mucho más

empatía merecen cercanía merecen homenajes y reconocimientos usted tiene que contar con las asociaciones de víctimas del terrorismo de eta no lo ha hecho no lo ha hecho tanto como debía durante los últimos tiempos

a unas víctimas con otras es decir no basta con grabar sus testimonios hay que hacer mucho más hay que hacer justo lo que usted no ha querido hacer durante todo este tiempo más cercanía

histórico corregir y tratarlas como se merecen es lo que nosotros le pedimos señor lehendakari gracias eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

yo no sé si su dedicación a las tareas del partido al que usted pertenece en el conjunto del estado le impide enterarse de lo que sucede en euskadi

y la permanente utilización partidaria e interesada de las víctimas de esta cuestión

ni comparto ni entiendo ese código y creo que la sociedad vasca tampoco para el juego de la demagogia señor maneiro no cuente conmigo

son los hechos y las actuaciones y a los hechos y a las actuaciones me remito al decirle si usted se entera realmente de lo que en esta sociedad vasca en esta comunidad autónoma del país vasco se está haciendo entre el conjunto de las administraciones

y también con las asociaciones de víctimas del terrorismo

mire un hecho real el último año hemos avanzado en el consenso en cuestiones de memoria o reconocimiento a las víctimas todos los grupos parlamentarios han participado en los actos de reconocimiento a víctimas celebrados el veinte de febrero y el once de marzo todos menos uno el suyo

el suyo es algo que debería hacerle reflexionar aunque claro usted como también dijo ayer que todas sus ideas buenas pensará que todas y todos los demás estamos equivocados

heltzeke daudela hori guk ere badakigu pero los datos de recaudación están ahí

que las previsiones de recaudación eran demasiado optimistas demasiado triunfalistas teniendo en cuenta que no había modificación alguna en la fiscalidad que apuntaran

multiplicar por más de tres el incremento de la recaudación real del dos mil quince que prever aumentar la recaudación en más de ochocientos ochenta millónes cuando en el dos mil quince ni siquiera había llegado a trescientos millónes era una imprudencia y ahora vemos cómo los datos de recaudación nos colocan frente a una situación

si los datos del dos mil quince supusieron un revés importante vemos que estos del dos mil dieciséis pueden suponer el anquilosamiento de una situación que no acaba de despegar por mucho que día sí y día también

en diferentes presentaciones y actos públicos con un crecimiento en la recaudación inferior al dos por ciento y unas previsiones económicas diremos complicadas el panorama presupuestario que se presenta para este dos mil dieciséis no parece que sea el que el gobierno preveía y por lo tanto

zuek aurreikusitakoa emango dutenaren zain resulta verdaderamente sorprendente que ante los datos de recaudación que vienen incumpliendo sistemáticamente sus previsiones aquellas previsiones grandilocuentes que hicieron cuando presentaron la contrarreforma fiscal

ni tomar en consideración las propuestas de otros grupos sino que han ahondado en ella han ahondado en el error como demuestra por ejemplo

que realizó la diputación de gipuzkoa zuen zerga

oinarrizkoak direlako ante la situación presupuestaria que se plantea es fundamental que sepamos cuál va a ser la posición de este gobierno cuál es la posición de este gobierno qué medidas prevé tomar ante la presumible reducción de ingresos que se va a dar en el ejercicio dos mil dieciséis

de las previsiones de recaudación de impuestos que ya se preveía a finales del dos mil quince

no esperen a hechos consumados no esperen al no nos queda más remedio actúen con previsión reasignen y prioricen de una vez por todas las políticas que la ciudadanía

no marcan nada bueno señor consejero nada bueno que estamos hablando de que la previsión es de un siete por ciento que estamos hablando de que estamos en un uno coma dos y lo peor no es eso lo peor es que los datos económicos no apuntan nada bueno

en el tema económico mundial las cosas no acaban de cuajar no digamos del estado ahí ya prefiero ni meterme y el tema de los carburantes

tan complicada como era cuando se hicieron estas previsiones en octubre que tampoco eran correctas como se demostraron ya en febrero yo

no son correctas son demasiado triunfalistas son previsiones hechas

demasiada alegría claro luego usted vendrá otra vez con la inejecución presupuestaria

han sido más de seiscientos cincuenta millónes los que no ha ejecutado este gobierno eso no es una inejecución técnica

trescientos bueno a lo mejor pero seiscientos cincuenta millónes de inejecución técnica

y para este dos mil dieciséis ustedes van a dar órdenes y no nos lo quieren decir

de ralentizarlos o de dejarlos para más adelante y eso es lo que tienen que decir dónde van a hacer las cosas o si finalmente van a optar por hacer lo que tenían que haber hecho

insisto ustedes vuelven a decirme hay que cumplir la ley de estabilidad cosa que yo aquí no he dicho en ningún momento que no esté de acuerdo con controlar las cuentas

mire señor consejero yo desde un punto económico podría entender que el consejero de hacienda en su hoja de servicios diga he controlado el déficit porque es su quehacer yo lo entiendo desde un punto de vista económico

en su hoja de servicios como punto número uno ponga el control del déficit no lo entiendo no lo entiendo porque eso es un tema de usted es un tema de técnico y no es un tema de objetivo político no puede ser un objetivo político el control del déficit y lo he dicho por activa por pasiva y en chino mandarín en este estrado es una herramienta y no puede ser un objetivo político

de este gobierno el control del déficit para eso no hace falta ni gestionar ustedes no gastan y alegría y así no vamos a ningún sitio señor consejero así no vamos a ningún sitio insisten

siguen en su misma actitud de espera de espera esperan a que la economía mundial mejore esperan a que europa cambie de política esperan a que el gobierno de madrid reaccione inacción en estado puro no han hecho nada

fiscal de este país no han hecho nada por negociar el déficit no lo han hecho porque el día dieciocho de enero cuando ustedes acordaron o supuestamente acordaron se quedaron con el objetivo de déficit que había impuesto el señor montoro al resto de comunidades autónomas dónde está ahí el acuerdo

y otras instituciones no han podido hacer eso nunca ustedes sí ustedes estuvieron allí y qué acordaron lo mismo que el resto de comunidades autónomas akordioa hor non

eta ia ia gezurretan nengoela esan zidaten lo advertí no estaba acordado

lehendakari señor consejero miembros del gobierno quiero trasladarles resumida la muy

de dos mil dieciséis bases para el debate social sobre la pobreza energética en euskadi y se la traslado ahora en primavera para que el gobierno vasco pueda con tiempo una estrategia global contra la pobreza energética porque es precisamente eso lo que necesitamos una estrategia global que luche contra la pobreza energética en lugar de poner en marcha diversos parches que traten de hacer frente a esta lacra

ante serias dificultades para poder mantener una temperatura adecuada en su casa durante los meses fríos el ararteko su recomendación general en concreto más de un diez por ciento de la población la encuesta de necesidades sociales dos mil catorce sobre pobreza documento que elabora el departamento de empleo y políticas sociales del gobierno vasco a fin de analizar los distintos indicadores de pobreza

incorpora dos datos que han sufrido un incremento significativo en el periodo dos mil ocho dos mil doce el número de personas que tienen problemas para mantener su hogar a una temperatura adecuada durante los meses fríos ha alcanzado en dos mil catorce a doscientos treinta y cinco mil quinientos veintiséis personas cuando en dos mil ocho no llegaba

por otro lado en dos mil catorce la población afectada por cortes de suministro de servicios energéticos en el hogar incluyendo agua o teléfono afectó a treinta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco personas frente a las treinta y cinco mil ciento noventa y uno

este indicador es conocido como pobreza energética principalmente aparece

de malas condiciones objetivas de la vivienda o del excesivo precio

energéticos la lucha contra la pobreza energética constituye una prioridad social que debe ser evaluada desde todos los ámbitos sociales se trata

específicas que acompañen a las políticas públicas e iniciativas sociales ya existentes con el objetivo de reducir y paliar los efectos de este fenómeno que afectará

y vascas este próximo invierno la pobreza energética se caracteriza en particular

para poder acceder a unos estándares básicos de energía en sus hogares

a la ciudadanía tener una vida digna y que tiene naturaleza

el derecho a disfrutar de una vivienda adecuada la dificultad de las personas para el acceso a un suministro energético adecuado no es un fenómeno en nuestro entorno países como el reino unido irlanda o bélgica vienen abordando este fenómeno específico con el objetivo de poner en práctica medidas específicas para su contención los elementos específicos de este fenómeno tienen en cuenta que la precariedad de recursos energéticos no está únicamente relacionada con la situación económica de las personas

con las condiciones objetivas de los hogares también con las condiciones del mercado de suministro de servicios energéticos así las cosas la pobreza energética no afecta

a otros colectivos factores que tienen incidencia el incremento de la factura energética la crisis económica y la reducción de la renta

el incremento en el consumo energético doméstico la realidad es que nuestra sociedad requiere hoy en día determinados servicios energéticos para alcanzar los estándares adecuados

la obsolescencia energética del parque de edificios y viviendas la oportunidad de las energías renovables y de la gestión energética descentralizada y evidentemente las políticas sociales destinadas al pago de la factura

inciden en esta cuestión cuáles son las consecuencias de la pobreza energética y quiero resumirlas porque de esto evidentemente se podría hablar evidentemente efectos sobre la salud efectos sobre la calidad de vida y el bienestar efectos especialmente para los consumidores más

o electricidad hasta poder realizar el pago de los gastos atrasados los efectos también sobre el medio ambiente

este fenómeno conocido como pobreza energética requiere una respuesta específica mediante un plan de acción concreto para tratar de prevenirla y paliar sus efectos concretos por lo tanto un plan de acción concreto

importante para la toma en consideración de este problema energético lo ha dado la unión europea mediante la aprobación de una serie de directivas comunitarias dirigidas a regular el sector energético y promover medidas de ahorro y eficiencia energética en las que expresamente se considera el fenómeno de la pobreza energética no me pararé

una serie de medidas todas ellas en todo caso insuficientes en nuestra comunidad autónoma hasta hace pocos años la pobreza energética ha sido un fenómeno relativamente

la pobreza energética ha venido adquiriendo mayor entidad fíjese lo que dice el ararteko en su recomendación a pesar de ello hasta la fecha las administraciones públicas vascas no han sido capaces de desarrollar una estrategia global específica

a la pobreza energética y es precisamente esto lo que nosotros venimos a pedirles una estrategia global específica no parches no medidas sueltas sino una estrategia global que haga frente a este fenómeno podemos

adoptadas con el fin de paliar o prevenir este fenómeno así como otras medidas más recientes llevadas a cabo hasta la fecha para responder de forma específica a la pobreza energética en euskadi porque se han hecho cosas efectivamente en los últimos tiempo

para paliar la pobreza energética dentro de las políticas sociales medidas estructurales para prevenir la pobreza energética mediante políticas de rehabilitación

existentes medidas estructurales para prevenir la pobreza energética mediante políticas de información y asesoramiento a los consumidores energéticos

de la pobreza energética tanto el parlamento vasco como el gobierno vasco han acordado una serie de iniciativas y medidas económicas para tratar de paliar este fenómeno

exigiendo medidas a este gobierno sin embargo a pesar de que se han tomado medidas por parte de este gobierno por parte de esta cámara por parte también de

están siendo claramente insuficientes y por lo tanto yo lo que les pido fundamentalmente es una estrategia global

a este fenómeno porque lo que se ha hecho hasta ahora ha sido claramente insuficiente creo que este gobierno ha actuado tarde

no ha tenido una estrategia global ha actuado a impulsos de las exigencias planteadas por este parlamento se han producido retrasos en el pago de determinadas ayudas y creo que ha imperado la insensibilidad y el conformismo como si este asunto fuera un asunto

señor lehendakari señor consejero es qué es lo que va a hacer este gobierno en el futuro para

a la pobreza energética en euskadi algunas cosas ya se han hecho en los últimos tiempos pero han sido decisiones digamos aisladas sin conexión

del ararteko y si consideran que las medidas que él plantea pueden ser tenidas en cuenta por este gobierno con un objetivo fundamental y es que no haya pobreza energética en euskadi que seamos capaces todos de poner en marcha una estrategia global para hacer frente a este fenómeno

evidentemente hace falta una estrategia global y el compromiso de este gobierno o del gobierno que venga en breves fechas nosotros lo planteamos porque nos parece que es un asunto

y también en la recomendación general del ararteko como usted ha hecho referencia señor maneiro ambos informes recogen que el sistema de renta de garantía de ingresos prestaciones de vivienda y ayudas de emergencia social está teniendo también un impacto muy positivo

más graves de la pobreza en muchos casos es más en el informe de la recomendación del ararteko se recoge este sistema de protección

para paliar la pobreza energética dentro de las políticas sociales sin dejar de abordar de manera integral las situaciones de pobreza

en materia ya de pobreza energética a la que hace referencia esta interpelación estas medidas específicas se han puesto en marcha a raíz precisamente de dos mandatos

en cumplimiento de estos mandatos parlamentarios el departamento de empleo y políticas sociales se ha esforzado en habilitar medidas conducentes a que ningún ciudadano o ciudadana de euskadi que se encuentre en situación demostrable de no poder hacer frente a sus facturas en especial en épocas de mayor demanda

de gas o de agua sobre todo de calefacción el presupuesto del año dos mil quince tuvo

vale insuficiente el de dos mil dieciséis de cuatrocientos mil euros

para encauzar estas situaciones y con el objetivo de paliar las necesidades más inmediatas de las familias en situación vulnerable o en riesgo de exclusión

para apoyar también a las familias afectadas por la crisis como respiro económico

otras necesidades e intentar solventarlas el dos mil quince firmamos un convenio entre la cruz roja y el gobierno vasco

en lugar de hacerlo a través de un convenio que se demoró más de lo previsto

por nuestra culpa se va a vehiculizar a través de una orden del consejero que se puede firmar tan rápido como sea posible en este convenio

los términos de colaboración se recogían cómo se iban a efectuar las ayudas a las familias afectadas cruz roja dependiendo de la valoración realizada individualmente facilitará facilitaría a las familias

suministros y acompañamientos para la adquisición de habilidades con talleres de gestión y ahorro doméstico que también a veces nos faltan estas habilidades

porque es importante que a raíz del mandato parlamentario una vez más el departamento de empleo y políticas sociales se puso en contacto con las principales empresas energéticas

que suministran electricidad y gas

creo que puedo calificarlo como bueno muy bueno esperanzador ya que estas tres empresas se comprometieron a cuatro cosas en primer lugar se mostraron favorables a llegar a acuerdos y a renegociar las deudas con las familias

manifestaron su voluntad de paralizar los procesos de suspensión de suministro de electricidad y gas si se hubieran producido en tercer lugar se comprometieron a restablecer el suministro en el caso de que ya se hubiese suspendido evidentemente por impago

y en cuarto y último lugar se comprometieron a asesorar informar y formar a la cruz roja sobre distintos aspectos para que a su vez se

ha firmado directamente con cruz roja un acuerdo para agilizar y facilitar la forma de pago a las personas usuarias de servicios sociales por deudas

para abordar el tema de la pobreza energética tenemos que tener en cuenta una perspectiva más amplia que el de las políticas sociales tal y como bien recoge el ararteko en su recomendación es por eso que en esta interpelación también le explicaré

hemos venido desarrollando en la recomendación del ararteko tanto en el análisis de la situación en los principios que se deben tener en cuenta a la hora de definir medidas contra la pobreza energética como también en las medidas propuestas se hace referencia a la mejora de la eficiencia energética

en este ámbito venimos desarrollando desde el dos mil trece el plan renove rehabilitación en el que en dos de sus cinco líneas de actuación se aborda el programa de ayudas a particulares y comunidades de propietarios para la rehabilitación de edificios

para la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado

las actuaciones protegibles son dos por una parte la adecuación estructural

parte la intervención en la envolvente térmica importante para la eficiencia

una de las actuaciones que se protege es precisamente la de la reducción energética a través de la envolvente en instalaciones de producción térmica para conseguir como mínimo una certificación energética cien

hay que añadir la nueva inspección técnica de edificios que también digo repito también menciona el ararteko

doscientos cuarenta y uno barra dos mil trece la ite es un instrumento

de todo el edificio y en segundo lugar y es a lo que nos referimos específicamente en este caso a garantizar la eficiencia energética de la vivienda

ayudas a la rehabilitación eficiencia energética y accesibilidad nuestro parque de vivienda como usted conoce señor maneiro está

tiene en muchos casos más de cincuenta años estas

desde el departamento estamos insistiendo contundentemente seriamente en que se empiece a exigir las

porque sabemos que esto es bueno también para el ahorro de los hogares para el ahorro energético orain egiteko asko daukagula onartzen dut

sí gracias señor consejero se han tomado una serie de medidas en los últimos tiempos ciertamente pero creo que son medidas que se toman de manera

dispersa o individualizada en lugar deponer en marcha diseñar poner en marcha una estrategia global sobre la cuestión no sé si usted considera que este gobierno tiene una estrategia global perfectamente diseñada para poner en marcha

a la pobreza energética me gustaría que me pudiera responder a esto si efectivamente existe una estrategia global que es lo que se necesita

ararteko porque todas esas medidas están relacionadas y son muchos los factores que inciden en la existencia de la pobreza energética el incremento de la factura energética

de la renta de las personas el incremento del consumo energético el parque de edificios y viviendas las energías renovables y la gestión energética y por último las políticas sociales a veces nos centramos únicamente en este último punto pero todo ello tiene incidencia y las medidas que se pongan en marcha deben ser coherentes unas con otras y creo que deben formar parte todas ellas estrategia global el ararteko lo dice claro hasta la fecha las administraciones públicas vascas no han sido capaces de desarrollar una estrategia global específica para hacer frente a la pobreza

quizás porque sea un fenómeno nuevo quizás porque sea difícil poner en marcha todas estas medidas quizás por insensibilidad de este gobierno o por falta de coordinación de las diferentes instituciones pero es una realidad que queda mucho por hacer y usted mismo lo ha reconocido mire los principios que señala el ararteko

principio de especialidad de la lucha contra la pobreza energética principio de intervención en favor de los colectivos vulnerables principio de garantía de acceso a unos suministros energéticos básicos o vitales para la ciudadanía principio de prevención de la exclusión

principio de ahorro y reducción en el consumo principio de información sobre medidas de ahorro energético los poderes públicos deben poner los medios suficientes para garantizar

sobre el consumo real las modalidades de contrato de potencia más convenientes para cada cliente y sobre las medidas apropiadas para la reducción del consumo energético mediante el cambio

principio de sostenibilidad de las medidas principio de intervención pública principio de concertación social principio de participación ciudadana todos ellos muy interesantes esta recomendación del ararteko

todo lo que debería hacerse en relación a esta cuestión y plantea una serie de medidas en diferentes ámbitos por ejemplo en el ámbito de regulación del sector de la energía

más vulnerables plantea el establecimiento de un plan de lucha contra la pobreza energética en euskadi y la definición del consumidor energético vulnerable

pobreza energética y medidas también dirigidas a la protección del consumidor energético más vulnerable como

vulnerables o el derecho a la información adecuada desde la perspectiva del consumidor energético más vulnerable y una serie de medidas para mejorar la eficiencia energética en los hogares

por pobreza energética como llevar a cabo auditorias energéticas para los clientes más vulnerables o el estudio de la eficiencia energética del parque de viviendas de protección pública o las ayudas a la rehabilitación energética dirigidas a los colectivos más vulnerables y una serie también de medidas sociales para paliar

energética es decir una serie de medidas dentro de diferentes ámbitos que conformarían todas ellas pues esa estrategia global que pediremos al gobierno que presente en las próximas semanas

a la pobreza energética pero hace falta una estrategia global no hace falta que haya un partido político que incluya

diseñar y poner en marcha una estrategia global

energética sabemos ya mucho de ello sabemos lo que se ha hecho sabemos lo que queda por hacer sabemos cuáles son las medidas necesarias el gobierno tiene que ponerse a ello este gobierno hasta la fecha que sea señor lehendakari y el que venga después

de manera integral y debemos reconocer que aun siendo mejorable el sistema de garantía de ingresos está resultando eficaz seguramente nunca totalmente eficaz pero eficaz

de pobreza en miles de familias vasca y que afortunadamente eso permite

no aparezca como tal insisto también que sin perder de vista esta perspectiva integral se están poniendo en marcha medidas específicas para hacer frente a la pobreza energética

de las medidas de política social como a través de las políticas de vivienda le recuerdo convenio firmado con cruz roja en la que se facilitan a las familias recursos y muy importantemente también recursos organizativos como la información y el desarrollo de habilidades de gestión doméstica que tanta falta nos hacen a muchos de nosotros a los que necesitan

aunque no lo necesitemos económicamente únicamente con este convenio se avendría con varios de los diez principios que recomienda el ararteko y que usted cita a tener en cuenta a la hora de elaborar planes contra la pobreza energética

sobre medidas dirigidas a la protección del consumidor energético más vulnerable

para paliar los efectos de la pobreza energética sin olvidarnos tampoco del trabajo de concienciación y sensibilización que se ha realizado con las empresas

el plan renove rehabilitación hasta el momento y desde el año dos mil trece a través del programa de ayudas uno y cuatro concretamente ha destinado

para mejoras relacionadas con la eficiencia energética de las que se han beneficiado dos mil seiscientos cincuenta y cinco viviendas

las otras cifras eran del dos mil trece al dos mil quince ocho coma uno millónes de euros se destinarán por la que esperamos que se beneficien casi

no me gusta porque no debemos ser autocomplacientes nunca nunca

el ararteko en su recomendación nos propone cuatro bloques de medidas con las medidas puestas en marcha hasta el momento creo que podemos afirmar que disponemos de una base importante para poder profundizar en la prevención de la situación de pobreza energética en particular y de las situaciones de pobreza en general

tenemos que seguir colaborando con las entidades sociales sensibilizando al sector energético y rehabilitando con criterios de eficiencia energética nuestro parque edificado

sin duda ninguna si la pide este parlamento al gobierno como no puede ser de otra manera y además haciendo propia la voluntad del parlamento el gobierno redactará escribirá ordenará las medidas que viene haciendo en materia de

pero le tengo que decir que las medidas que se toman desde el gobierno son coherentes que se toman desde el mismo departamento casi todas ellas aunque no todas empleo

que no están redactadas de manera global vale creo que en este caso si hay un mandato parlamentario de recogerlos de manera formal

es mucho más importante que nuestras familias realmente estén protegidas de la pobreza energética
que este parlamento o que este gobierno tenga formalmente redactada una estrategia sin duda lo haremos si este parlamento lo solicita eskerrik asko eskerrik asko toña jauna

una pregunta en relación al empeoramiento de la economía había elementos signos datos a nivel internacional también a nivel nacional también a nivel de euskadi

persiste hoy la pregunta está relacionada con esa caída de la recaudación en los dos primeros meses

que aunque ya ha sido interpelado aquí

justificaciones para decir por qué está ocurriendo esto yo lo hago en un sentido diferente no lo quiero utilizar como un arma arrojadiza sino como

y de una responsabilidad o corresponsabilidad que tenemos con el funcionamiento institucional y también con la política económica y social

nosotros estamos implicados en la política presupuestaria y en muchos de los objetivos políticos que esa política presupuestaria conlleva y por lo tanto la recaudación afecta a la posibilidad de que se desarrollen esos objetivos

en el que se plantea que en el año dos mil quince se han reducido de una forma importantísima tanto las inversiones como el desarrollo económico y obviamente reduciendo

y desarrollo de las inversiones la recaudación se tiene que resentir yo recuerdo unas afirmaciones del señor gatzagaetxebarria que se las atribuyeron a él están publicadas en las que se hablaba de bueno esperemos al mes de abril y

si es necesario hablaremos de recortes con las administraciones

nuestro compromiso político no está con los recortes está con el desarrollo económico del empleo de las políticas sociales de los servicios públicos

hace un par de meses le preguntaba qué medidas tiene pensadas para un empeoramiento de la economía

para corregir esta tendencia a la baja de la recaudación porque el autogobierno permite hacer políticas

permite hacer políticas en la corrección de la fiscalidad en la lucha contra el fraude fiscal en el desarrollo económico en el desarrollo del consumo hay una capacidad extraordinaria de política y ante esto no se puede permanecer impasible y no se puede estar expectante exclusivamente

yo le invito a que hoy aquí nos pueda hacer partícipes de cuáles son las preocupaciones las previsiones que tiene a este respecto sobre este empeoramiento de la economía

es diseñar un objetivo y tratar de conseguirlo es convertir aquello que es una preocupación en algo que es una solución

de los últimos acontecimientos porque esto ya está hecho sino lo que le estoy diciendo es su gobierno qué medidas va a tomar qué medidas va a tomar ante el empeoramiento de la economía que trastoca los planes que en un principio estaban planteados

yo entiendo que en estos momentos ustedes se están colocando en una situación de una cierta provisionalidad porque desde luego mezclar objetivo presupuestario con unas elecciones anticipadas mezclarlas con una incapacidad para hacer un gasto en el desarrollo económico o en las inversiones

mucha incertidumbre sobre la capacidad política y la voluntad política de este gobierno

qué va a hacer para corregir todo esto que pesa negativamente

a pesar de su corta respuesta yo le diré que esta legislatura se ha caracterizado por el fracaso absoluto en materia de políticas de cooperación y no es que además se lo diga este grupo no es que se lo diga euskal herria bildu es que se lo dice además

de euskadi que aglutina a más de setenta organizaciones

y se lo digo porque ustedes a lo largo de esta legislatura han hecho los mayores

de dos mil dos señor lehendakari hace pocos días hemos tenido frente a esta cámara una concentración de la propia coordinadora

titulado parlamiento porque los múltiples mandatos parlamentarios que se han aprobado en esta cámara incluso propuestas como las orientaciones

con el engaño de decir que estaban garantizadas ya en los presupuestos no han sido verdad ha sido falso señor lehendakari

como el plan director de cooperación tanto en contenido como en recursos para ello en este periodo presupuestario han destinado o van a destinar cuarenta y tres

que esta cámara por mayoría con la propuesta del propio gobierno en el plan de cooperación había previsto para este periodo presupuestario

este presupuesto pero digamos la verdad a la ciudadanía digamos que de esos cuarenta y tres millónes de euros solamente para el periodo dos mil dieciséis hay ocho millónes de euros porque lo demás señorías está comprometido de años anteriores

de periodos de años anteriores y para este año hay ocho millónes lo que le va a llevar a la propia agencia vasca de cooperación a no poder sacar convocatoria de proyectos para este periodo es absolutamente vergonzoso en materia de cooperación ha sido un fracaso la política de este gobierno y es necesario ponerlo de manifiesto y dejar muy claro que

ante esa evaluación de los mil días de gobierno que hacía en pasados días

podemos incluir la cooperación dentro de este noventa por ciento con un plan que no han cumplido pero que les ha servido para hablar

en materia de cooperación han aprobado también un informe que ha presentado

y que ese informe tendría que titularse informe de incoherencia de políticas para el desarrollo

en esta cámara por quienes han presentado el informe por las múltiples incoherencias que todas las áreas de este gobierno han tenido en materia de cooperación

no vaya por la vía que tendría que ir acorde con los valores que han caracterizado a la cooperación vasca

por favor que sea sincero por una vez en la vida admita que en materia de cooperación han cometido muchos errores en esta legislatura y que precisamente esta legislatura no se va a caracterizar por el cumplimiento de la ley vasca de cooperación

que se viene incumpliendo de forma reiterada pero es que ahora estamos en niveles absolutamente vergonzosos inferiores

a otros periodos como puede ser dos mil doce cuando teníamos un cero coma cincuenta y dos por ciento que no eran lo que establecía la ley pero se acercaba pero es que ustedes se han encargado de acabar con las políticas de cooperación paulatina pero acabar con

joan den asteazkenean herenegun a usted evidentemente le parece

literalmente de lo que es la ley vasca de cooperación nosotros

estamos actuando y tendrá que reconocer una realidad incontestable primero este gobierno no oculta la verdad no hemos ocultado las dificultades presupuestarias que hemos tenido que padecer

cada ejercicio presupuestario en esta legislatura segundo a pesar de las dificultades este gobierno se comprometió a mantener todos los programas de cooperación en marcha

y a pesar de estas dificultades este gobierno se comprometió a incrementar anualmente las dotaciones presupuestarias a cooperación y lo hemos cumplido y no en la medida

pero sí por encima del incremento presupuestario general y en un momento en que se está desmantelando la cooperación descentralizada en el estado tendrá que reconocer una realidad euskadi representa el cinco por ciento de la población del estado y el treinta y cinco por ciento de los recursos destinados a cooperación descentralizada en el estado corresponden a euskadi me habla de la coordinadora a la cual respeto pero también creo que merece reconocimiento el consejo vasco de cooperación al desarrollo donde todas estas cuestiones

por lo tanto señora urrea nuestro compromiso con la cooperación al desarrollo es claro lo estamos demostrando año a año estamos poniendo toda nuestra capacidad avanzando en el cumplimiento de la ley

euskadi es una sociedad solidaria y en los últimos años se está haciendo además un gran esfuerzo en las políticas de solidaridad y de cohesión interna de cohesión interna

que también a nuestra sociedad está afectando y quiero poner en valor que la política de cooperación de euskadi está introduciendo también un elemento fundamental a mi juicio

todos los ámbitos del gobierno este es el compromiso realismo y sostenibilidad futura eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamargarren puntua galdera

señala la existencia de suficientes indicios para acusar de cinco delitos

de salud en la contratación de diversos servicios sanitarios del gobierno de ibarretxe

que afectaban a procesos de contratación sin publicidad concurrencia cómo se incrementaron los precios aplicaron subidas de tarifas para beneficiar a las mismas empresas a pesar

como se creó una empresa ad hoc gestión de servicios sanitarios veintiuno para la gestión de listas

prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido autorización declarada nula de pleno de derecho y cómo se produjo un perjuicio económico el citado auto de instrucción se puede decir que va en la misma línea habla de dicho procedimiento de autorización

cómo se concedió la autorización y se emitió en el mismo día en que fue solicitada cómo fue declarada

cómo existe un lucro y beneficio económico de los investigados cómo se favoreció a esta sociedad y a los investigados de las adjudicaciones públicas que no debían haber recibido

elevadas cantidades de fondos públicos que no tenían que haberse producido como decía aumentándose las cuantías

y concurrencia lo que es llamativo y absolutamente inusual señor lehendakari es que el consejero actual

y otros ex altos cargos del departamento de sanidad concretamente diecisiete entre los que también estaba el señor viñegra actualmente viceconsejero firmaran con absoluta prepotencia

por encima del bien y del mal un escrito en el que se negaban las acusaciones

se habla de pasada de las filtraciones a las que usted ha hecho referencia pero es un escrito desde luego que se entromete e insulta claramente a la labor que estaba desarrollando este parlamento en una comisión de investigación habla de que se ensuciaba a toda costa al equipo anterior

acusaciones de corrupción que sin justificación alguna se habían vertido sobre nosotros

el gobierno vasco en la pasada legislatura se personó y el gobierno actual parece ser que

el gobierno vasco y el lehendakari esta mañana nos ha dicho que decide mantener la personación para defender el interés del gobierno vasco por encima de cualquier opinión entenderá señor consejero que nosotros pensamos que existe una clara contradicción

en dicho manifiesto absolutamente carentes del mínimo rigor ético fueron vertidas entre otros por el actual consejero de sanidad y viceconsejero miembros de su gobierno ese que usted dice que va a defender el interés general de los vascos por eso entenderá que le preguntemos qué criterio va a adoptar el gobierno para reparar los perjuicios ocasionados

por encima de las circunstancias de comisiones parlamentarias de legislaturas anteriores y sobre lo que pudieran ser manifestaciones que en su momento se pudieran verter sobre esas cuestiones le contesto

en la causa conforme al mandato parlamentario que así lo requería y en cualquier caso las actuaciones que en este campo desarrolle el gobierno se ajustarán a la técnica jurídica y se concretarán en el momento procesal oportuno no resulta por lo tanto señora garrido pertinente adelantar disquisiciones valorativas por un elemental

de las personas señora garrido dejemos actuar a la justicia dejemos actuar a la justicia como en repetidas ocasiones escuchamos a los dirigentes de su propio partido la última la vicepresidenta del gobierno español la señora soraya sáez de santamaría todavía yo la escuché

dejemos actuar a la justicia esto es lo que corresponde
declarar a una persona con responsabilidad institucional eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

y el gobierno que preside la acusación en este caso cuando usted tiene entre sus filas un consejero que en su día suscribió un manifiesto apoyando sin censuras a las personas investigadas y negando cualquier tipo de irregularidad

investigadas entenderá que tengamos dudas razonables y justificadas sobre la falta de credibilidad de su gobierno en esta materia

vamos a seguir personados en la causa en defensa del interés general y vamos a dejar actuar a la justicia para que emita un veredicto un veredicto que es sobre el caso en cuestión

en legislaturas anteriores sobre lo que era el funcionamiento de una comisión de investigación parlamentaria y en función del veredicto del proceso judicial actuaremos en consecuencia yo le voy a explicar a usted algo que ya conoce y usted ha hecho referencia a ello

al que usted ha hecho referencia en esta última intervención no es un auto acusatorio

no se trata de una acusación judicial reservada en su caso para un momento posterior sino que es estrictamente el resultado de la instrucción

reitero solo le pido coherencia le pido que apliquen ustedes lo que para sí demanda dejemos actuar a la justicia

los juicios políticos paralelos huyamos de ellos señora garrido eskerrik asko lehendakari jauna

es una buena idea porque puede traer algún tipo de objetivos

persigue en interés del preso pero habla usted también de alejamiento y es eso una cosa que me preocupa y por eso también le quiero cuestionar según dice los presos no deberían de estar a más de cuatrocientos o quinientos kilómetros de su lugar de origen es esto también algo que parece que usted dice y yo veo que esta no es la posición que mantiene o que aprobó este parlamento yo creo que esa es la posición

cuando alumbró cuando concibió cuando propuso la política de dispersión y creo que ha ido a madrid precisamente a justificar o a exponer cuál era aquella

visión crítica también del pasado del pnv según su ocurrencia de los cuatrocientos ó quinientos kilómetros para usted estaría mal que un preso vasco esté en herrera de la mancha es decir ciudad real pero estaría bien

toledo estaría mal porque está más allá de ese límite que usted pone de los quinientos kilómetros en castellón pero estaría bien que se encuentre en teruel estaría mal en lugo pero estaría bien que se encuentre en león lo que le quiero preguntar si la propuesta que hace el pnv o el gobierno vasco

es un acercamiento en toledo en teruel o en león

de los dieciséis familiares que han muerto por esta política trece de ellos lo han hecho a menos de quinientos kilómetros de cercanía de su casa es decir con su propuesta

muertes y le pregunto si asume

la dispersión es una medida arbitraria y que vulnera derechos humanos y la propuesta que parece que usted explicó en madrid es arbitraria

le pido encarecidamente que no retorzamos lo que yo hubiera podido decir en madrid que no fui a decir lo que usted dice que fui a decir y le pido que atienda lo que he dicho en mi primera intervención mire en este parlamento vasco desde mil novecientos noventa y siete y no es una ocurrencia mía hablar de los cuatrocientos ó quinientos kilómetros

de presos era uno hoy es otro en aquel momento la capacidad de las cárceles vascas era una hoy es otra diferente en función del cupo de presos

hice referencia en relación a que desde cuándo estamos hablando también los partidos políticos en la comunidad autónoma del país vasco sobre el acercamiento

a las cárceles más próximas a su lugar de origen o de residencia hemos defendido siempre además la necesidad de que las personas presas tuviesen garantizada su capacidad de tomar decisiones

para acceder a beneficios penitenciarios y favorecer la reinserción y esto es precisamente lo que ahora veinte años después han admitido los treinta y cinco encausados

son ustedes quienes han cambiado de opinión yo no he cambiado de opinión el gobierno sigue defendiendo

articular un proceso de acercamiento de presos y presas a cárceles

y sigo no existe impedimento legal para proceder al traslado a cárceles en la comunidad autónoma vasca

y contribuiría decididamente a la normalización de la convivencia hau da gure iritzia

con dos reclamaciones que el resto de los parlamentarios considerábamos necesaria

sus propuestas y planes de formación para quienes se ven afectados por la paralización temporal de sus empresas para estar mejor preparados a cualquier adecuación para los nuevos planes de viabilidad el remate de las dudas vino hace tres semanas cuando la consejera arantza tapia

una resignación que no entendimos nadie tampoco los afectados tan es así que tres días después el lehendakari anunció

como si de la noche a la mañana se idearan las cosas y que resulta que no era nuevo que ya lo tenía el gobierno de hace seis meses y lo había traspapelado usted

yo me pregunto si es la percepción que tienen las más de seiscientos familias que

o en estos momentos todos los habitantes de zumarraga ante la postura de arcelormittal y desde luego niego tajantemente que este gobierno

los socialistas creemos que sí tiene competencias para afrontar todas las consecuencias de decisiones que se adoptan fuera de aquí y le pregunto si piensa hacer uso de ellas eskerrik asko

voy a decir que en la crisis del acero y la afección que está teniendo en diferentes empresas del sector

y más allá de sus competencias y no hemos empezado ayer llevamos tiempo planteando soluciones y alternativas y lo hemos hecho ante el gobierno español también ante las instituciones europeas y más allá de políticas testimonialistas que son fáciles de plantear de proponer

para afrontar la realidad el gobierno vasco ha propuesto iniciativas concretas sí a las instituciones europeas para actuar contra el dumping chino y también ha propuesto al gobierno español

en su intervención inicial esta mañana estamos además particularmente con los propietarios con las direcciones de las empresas y con los comités de empresa así también como con los representantes institucionales de los municipios

de los territorios afectados estamos afrontando la realidad nos hemos implicado y nos seguiremos implicando nuestro único objetivo es ayudar a las empresas

el cierre definitivo de las plantas en euskadi superamos la crisis del sector naval trabajando conjuntamente y superaremos también

lo haremos con el sector del acero en su globalidad eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna azkue jauna zurea da hitza

lehendakari arcelormittal no saben dónde está zumarraga los que estamos aquí sí

que a ustedes esto les ha pillado con el pie cambiado les ha hecho tener que hablar de algo que no estaba previsto

que desgraciadamente han copiado en relación al empleo olvidándose

la de todos no excuso la nuestra por eso los socialistas hemos propuesto planes de dinamización

cuya continuidad depende de las decisiones que se toman lejos de euskadi lo hemos propuesto y a ustedes no les ha parecido urgente discutir de eso

el compromiso con sus empresas a sus familias y a las comarcas donde desarrollan sus vidas y hoy sabemos que podemos hacerlo acuérdese de los años ochenta hallando las consecuencias y al menos garantizando

de cambios que fueron oportunos a quien le corresponde tomar la iniciativa y el liderazgo es a usted le va a quitar algo de tiempo quizá en su campaña electoral

no diciendo nada concreto por cierto ayer y hoy compromiso con las personas y mañana llene por favor la propaganda de contenido

amurrio requieren rigor y la propaganda el autobombo molesta lehendakari a los que tienen su vida en un puño de incertidumbre apoyamos la manifestación que unitariamente los sindicatos han convocada

en defensa de nuestra industria defiéndala usted también

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor azkue yo no sé qué parte de mi intervención en la que reiteramos cuál es nuestro compromiso y desde cuando estamos

no se ha entendido reitero llevamos meses trabajando en esta cuestión y hemos puesto alternativas encima de la mesa nosotros y estamos trabajando con la representación sindical alcaldes y también con los responsables de las empresas y hoy sí mi mayor preocupación es la situación de la empresa arcelormittal que ha ratificada

vamos a insistir ante el grupo empresarial para que no abandone la comarca que el cierre temporal parcial de la planta de zumarraga no se convierta en definitivo y pedimos la máxima sensibilidad social con las familias afectadas que la empresa apueste por el conjunto de plantas productivas que tiene en euskadi

planes de inversión y modernización para su viabilidad y competitividad futura y en ese compromiso de futuro con el sector del acero trabajará y colaborará el gobierno vasco también el conjunto de instituciones me preocupa sí el conjunto de las comarcas afectadas no solamente zumarraga el conjunto de las comarcas afectadas el compromiso del gobierno a favor de su reindustrialización y recuperación económica es pleno

buenos días gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros señora consejera le interpelo en nombre del grupo popular sobre la situación del sector remolachero en la comunidad autónoma vasca

o principalmente no totalmente en el territorio de álava sector remolachero regulado por la

y si hacemos una breve historia hace diez años este sector ocupaba tres mil hectáreas de producción

suponía el treinta y cinco por ciento de los ingresos para estas explotaciones

uno de los cultivos más rentables el más rentable después de la uva y el vino es en el dos mil seis

modificación que se traduce principalmente en una reducción importante del precio por tonelada pasando de los cuarenta y ocho euros que decía a los veintiocho euros tonelada cuando los costes de producción estaban entre los treinta y ocho y cuarenta y uno euros tonelada de tal manera que la rentabilidad del sector queda en el aire el sector remolachero alavés es un sector

explotaciones bien dotadas en maquinaria y con regadíos que son imprescindibles para esta producción productores y administraciones han hecho muchos esfuerzos para que sea un sector competitivo y a la altura de las circunstancias o

más rentables que los productores de otras comarcas ante la situación que provoca la modificación de la ocm del azúcar gobierno vasco y diputación foral de álava junto con las asociaciones de productores de remolacha

elaboran el plan sectorial de la remolacha azucarera con el objetivo de promover actuaciones específicas orientadas a fortalecer y potenciar un sector el remolachero

una crisis coyuntural y que requería de unas atenciones preferentes este plan con modificaciones se ha mantenido hasta la entrada de la nueva pac que se basa en el reglamento el mil trescientos siete del dos mil trece

asociadas a determinados sectores y el gobierno de españa decidió que los remolacheros puedan recibir una ayuda asociada por hectárea de remolacha cultivada

esta ayuda según los datos del ministerio es de quinientos veintiuno coma treinta y tres

hay una diferencia importante por lo menos en los datos que hemos manejado y las fichas que su departamento tiene sobre esta ayuda en la que la ayuda asociada figura

entonces sí que me gustaría que nos explique esta diferencia señora consejera por qué esta diferencia

asociada qué valor es el que han pagado a los remolacheros en este ejercicio por ayuda asociada pero además

de ayudar por la medida de diversificación de cultivos extensivos

sostenible nos podría decir señora consejera cuál va a ser esta ayuda si está aprobada definitivamente por la comisión europea señora consejera no sé si se ha enterado de lo que le estaba preguntando

decía que los planes de desarrollo rural dan posibilidades de ayuda para la medida de diversificación de cultivos extensivos bajo técnicas de producción agraria sostenible

cuál va a ser esta ayuda en álava al sector remolachero de álava si está aprobada definitivamente por la comisión europea en qué términos está aprobada

es decir nos encontramos en los dos años de prórroga que se consiguió para la finalización de las cuotas dos años para ganar competitividad estamos en el comienzo

última campaña con cuotas y según los datos que dan las

porque aún no se ha empezado la siembra principalmente porque las lluvias lo impiden va a ser

y nos hemos quedado en ciento sesenta explotaciones es decir que en esta historia de diez años

no vamos a llegar a las dos mil hace diez años había cuatrocientos explotaciones y hoy hay

es verdad que las producciones y el buen hacer de nuestros productores

en rendimiento pero eso no es suficiente los datos de reducción de hectáreas y de explotaciones

este sector da muestras de debilidad hay que aprovechar los datos de los últimos rendimientos de nuestras producciones y centrar la atención en los costes de manera que obtengamos un beneficio mayor que genere oportunidades a los productores señora consejera desde el grupo popular

debe de trabajar y sentar las bases para garantizar el futuro del sector remolachero azucarero sin cuotas a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete

por un lado la ayuda asociada y por otro la ayuda regional todo esto también tiene que ir ligado

en algunos sitios por lo menos ya se ha comprometido me gustaría saber cuáles son los compromisos de la industria que afecta a la producción de álava si usted lo conoce si usted ha tenido

qué acuerdos está teniendo en las mesas de reunión que está teniendo con el sector sé que han tenido reuniones y me gustaría saber cómo afrontan en esas reuniones

señora consejera estamos hablando como le decía de un sector productor muy importante que afecta

que además de la parte económica supone la estabilidad de la población

hacen otra actividad complementaria por lo tanto señora consejera estamos hablando de un sector productivo importante y me gustaría sabercuál es su administración qué están haciendo junto con la diputación foral de álava y el sector

pero en qué escenario nos movemos o ante qué escenario como usted bien decía y

se analiza un documento propio de la comisión europea que habla de las perspectivas de los mercados agrarios en la unión europea dos mil quince dos mil veinticinco se observa que

van a tener un impacto muy importante tanto en el precio del azúcar que se espera que se aproxime al precio de mercado mundial

a que ese rendimiento sea mejor para poder seguir manteniéndose en el mercado se prevé además que en esa tendencia de precios a la baja

una mayor producción de azúcar en otros ámbitos en los que no se estaba produciendo

eso supone un cinco por ciento más de producción en general respecto a lo que se está produciendo en estos momentos en la unión europea

qué es lo que va a suponer además que para el dos mil veinticinco la propia unión europea

ese aumento bueno ante ese escenario qué nos proponemos y en qué estamos trabajando

debido a que las consecuencias para nuestro sector lácteo ya las hemos vivido y ya sabemos cómo las hemos sufrido es necesario que los agricultores en este caso alaveses solamente como decía nos dotemos de herramientas que faciliten el posicionamiento y el crecimiento sostenible de ese sector remolachero

en producción pero realmente lo que tenemos que conseguir cuando menos es que el crecimiento que podamos conseguir y aspiramos a un crecimiento sea además sostenible en el tiempo tal como usted decía además

auxiliada con fondos europeos de quinientos veinte euros por hectárea pero además me gustaría recordar que el propio gobierno vasco en el dos mil quince hemos puesto en marcha una ayuda minimis para ese cultivo de trescientos euros por hectárea ayuda del gobierno a la que también habría que añadir una ayuda puesta en marcha por ese mismo ejercicio por la diputación foral de álava pero además

diciembre de dos mil quince remitimos a la comisión como usted bien ha citado una nueva propuesta de medida de apoyo para ese cultivo dentro de las ayudas de desarrollo rural

medida que se encuentra en estos momentos en fase de negociación y por tanto no le puedo detallar en qué condiciones va a ser finalizada pero que esperamos poder establecer a lo largo de este mismo año dos mil dieciséis

y la aplicabilidad se extenderá como usted sabe también a lo largo de cinco años

de la parte correspondiente al gobierno vasco en este pdr y también me gustaría señalar que

nos ceñimos mucho a las ayudas que ponemos en marcha sí es importante señalar y también tenemos la experiencia del sector lácteo

que además de esas ayudas tenemos que articular otro tipo de medidas que hagan que el sector sea competitivo usted misma lo ha dicho evidentemente y de esa experiencia que hemos tenido con el sector lácteo que nos ha impactado evidentemente la liberalización pero que la crisis nos ha afectado de una forma más limitada que al resto precisamente porque el sector estaba mucho más estructurado y esa

por tanto dado que por una parte la alta productividad del sector de la remolacha en toda la zona norte del estado es cierto pero en álava desde luego lo estamos viendo de forma

tenemos que seguir trabajando en un escenario de estabilidad de seguridad entre el sector productor

en el acuerdo marco interprofesional que contribuya a mejorar esa competitividad del sector acercando y aprovechando oportunidades que se puedan abrir en ese nuevo escenario tratando un poco de diversificar el producto que podamos sacar de esa remolacha que es más difícil que la del sector de la leche es evidente pero que también tenemos que por tanto estamos tanto gobierno vasco diputación foral de álava y evidentemente nuestro sector remolachero para mejorar la sostenibilidad de los cultivos con un uso más racional de los factores de producción reduciendo diferentes costes

mejorando en cuestiones de fertilización de regadíos

productos fitosanitarios es decir todo aquello que nos permita mejorar la competitividad y la productividad de ese sector pero no vamos a quedarnos ahí porque evidentemente

y lo que vamos a hacer es sabemos que estamos en dos años de prórroga pero visto que

ha analizado qué es lo que ha ocurrido con el sector lácteo vamos a solicitar

a la unión europea diversas instancias que realmente consideren aumentar la prórroga y

tal y como se encuentran en estos momentos de tal forma que no solo a nosotros pero evidentemente también a nosotros

y a tenerlo preparado ante ese escenario de desaparición de cuotas es necesario que desde la propia unión europea se haga una gestión responsable de los mercados y que en ese nuevo escenario de cuotas tengamos condiciones sociales

que nos permitan ser competitivas y desde luego analizar qué es lo que está ocurriendo en terceros países y como nos afecta a la producción del sector de la remolacha en álava esa va a ser nuestra posición en estos momentos

de oportunidad para crecer en competitividad está claro que muchas veces no nos ponemos la

nos sentimos presionados y no sé si va a haber más prórroga pero yo aprovecharía la oportunidad

de producción nos están dando que cada año hay casi un diez por ciento de reducción de la superficie de producción casi un diez por ciento es mucho y las explotaciones se van reduciendo por lo tanto hay un

la producción ha subido sí un treinta y tres por ciento en los

excepto la campaña trece catorce más o menos que fue peor pero

y sin embargo el volumen de producción de superficie va a bajando por lo tanto tenemos que pensar que tenemos un sector muy profesional muy cualificado con unas estructuras potentes que tanto los productores como las administraciones han hecho un esfuerzo para que tengan las mejores condiciones para desarrollar su actividad

y por tanto tenemos que protegerlo y como decía usted y coincidimos todos volver a recuperar por lo menos un cierto volumen de superficie

y aunque llevemos cinco años con ese porcentaje conocemos datos anteriores y a veces bueno puede llegar a pasar por lo tanto creo que es muy importante que empecemos a hacer cosas y a dar pasos además usted sabe que hay

añadido el sector productor remolachero de álava depende de la planta de miranda

la planta de miranda queda pendiente por lo tanto estamos plenamente ligados totalmente ligados al volumen de producción y eso es una parte

yo les animo desde luego a que sigan trabajando y de manera más insistente si es posible para medidas de protección para este sector no de protección pero sí de fortalecimiento del sector y si es posible crecer que creo que es necesario

estamos preparados para ello pero vamos a hacerlos atractivos porque si se han dejado de sembrar es porque no están siendo atractivo para el productor por lo tanto señora consejera yo les animo a que trabajen si es posible de manera más insistente para que este sector vuelva a coger al menos el volumen de que teníamos hace diez años

presidente andrea estoy plenamente de acuerdo en lo que decía señora

tenemos que mejorar la producción tenemos que aumentarla y tenemos que hacer que sea atractiva

realmente esos productores tengan rendimientos que les permitan continuar con su actividad porque además todo ello va ligado como usted decía a la planta de miranda por lo tanto bueno yo creo que

qué más yo creo que hemos acordado y estamos haciendo pues bueno dentro de las posibilidades que nos permita además tener

el sector agrario mejorando la racionalización del uso del agua medidas que ya se están adoptando optimizar también la rotación de cultivos

nuevas técnicas de fertilización que nos permitan además que con menos costo tengamos rendimientos mejores que el trasporte que realizamos sea además más sostenible y más eficiente un mejor aprovechamiento incluso del subproducto que se pueda conseguir para bueno conseguir otros rendimientos

bueno en todos esos aspectos se está trabajando además de los que le he comentado previamente y desde luego nuestra intención es que este sector siga siendo competitivo que no se vea

que es el peor o el más realista en estos momentos nos estamos moviendo y desde luego no tenga usted la más mínima duda que vamos a trabajar con todas las instituciones y con el sector productor

para que este sector remolachero tenga futuro no solo hoy o mañana sino que sea un sector

eta nola ez ez dugu zehazki errekurritu denaren berri contra determinados preceptos de la ley de vivienda aditzera eman dutenez

sancionando su no ocupación erabiltzen diren argudioak izugarriak dira

una nueva regulación del derecho de propiedad sobre la vivienda

de manera concreta sucinta los artículos mencionados establecen la regulación de la vivienda deshabitada los instrumentos públicos de intervención en el mercado de la vivienda y los agentes intervinientes en la prestación de servicios inmobiliarios

y al objeto de fomentar el cumplimiento de la función social de la vivienda establece un canon que las gravará a estas viviendas además del canon podrá imponérseles el alquiler forzoso según la ley en aquellos ámbitos que haya una demanda de vivienda en alquiler acreditada si se mantienen vacías un año después

en cuanto a los instrumentos públicos de intervención en el mercado de la vivienda la ley ha regulado la expropiación forzosa de las viviendas libres para los casos en los que se incumpla el deber de conservación y rehabilitación

de viviendas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria o por arrendamiento finalmente

ha definido aquellos agentes que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios abriendo la posibilidad de regular requisitos para el ejercicio de la actividad del agente inmobiliario así como las obligaciones que estas personas deben cumplir el gobierno central consideró que la celebración de una comisión bilateral de cooperación administración estado administración de la comunidad autónoma de euskadi

un recurso de inconstitucionalidad no podía ser de otra manera y así lo hicimos el gobierno vasco

así se acordó a través de una resolución del treinta de junio del dos mil quince del viceconsejero de régimen jurídico designándose

la solución que procediera ya en el mes de octubre

que todavía no había sido convocada serían criterios de legalidad de la ley de vivienda de defensa de la ley de vivienda aprobada por mayoría de este parlamento y además manifestó el lehendakari que el ejecutivo vasco defiende que euskadi tiene pleno derecho

y que intentar coartar la capacidad de legislar y condicionar las políticas públicas es una injerencia del gobierno de españa que atenta contra nuestro autogobierno

posteriormente la dirección general de coordinación de competencias con las comunidades

nos convocó por fin a una reunión el doce de noviembre del dos mil quince al grupo de trabajo creado

porque no convocamos nosotros esa comisión y nos convocó nada menos más que para tratar además de la ley de vivienda que ya de por sí tenía bastante digo yo para una reunión

la ley de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking demasiados temas para una reunión

al texto aprobado por este parlamento que permitiera disipar las dudas que había trasladado el gobierno central

no puede ser en ningún caso modificado por la comisión bilateral queramos o no queramos pero es que además no queremos modificar una ley que ha aprobado este parlamento faltaría más

ezaren santzioa arautzen duen normatiba bertan behera uztearen ingurukoa da hasta la fecha hasta hoy hasta ahora el gobierno no ha recibido ninguna notificación sobre la interposición del recurso anunciado por el consejo de ministros por lo que desconocemos los fundamentos jurídicos como los artículos recurridos aunque los imaginamos

o si se ha solicitado la suspensión automática de los mismos debemos destacar que aquellos artículos de la ley de vivienda que no sean objeto del recurso están en vigor y por lo tanto son de aplicación no tenga ninguna duda de esto señora otamendi ninguna duda

todos sus efectos con la excepción en caso de suspensión de los artículos recurridos que serán como máximo un total de quince a los que antes he hecho referencia

son suspendidos y nosotros los trataremos de defender

a pesar de no tener una notificación oficial hasta el momento todo hace pensar

tal y como se anunció en esas garantías jurídicas del uso adecuado

es verdad que no ha sido una sorpresa para este gobierno la presentación del recurso de inconstitucionalidad

el ministerio de economía ya advirtió de las posibles causas de inconstitucionalidad que a su entender existían así como durante el desarrollo de la comisión bilateral muchas de las cuestiones que no hicieron posible el acuerdo con el partido nacionalista vasco en la aprobación de la ley de vivienda

con nuestras dudas en relación con la inconstitucionalidad de determinados preceptos que se estaban introduciendo en la ley y usted lo sabe señora otamendi lo sabe

con las tasas y otros que habrá que corregir seguramente a petición de esta cámara

además numerosas normativas de otras comunidades autónomas que han regulado aquellos aspectos cuyo recurso se han anunciado habían sido previamente recurridos

navarra el decreto ley de andalucía

la mayoría para euskadi lo he dicho lo repetiré y desde el primer día manifestamos que la ley aprobada por este parlamento es una ley que el gobierno hace suya que los partidos de la oposición hacen suya particularmente al menos el partido nacionalista vasco hace suya que desarrollara el gobierno y aplicará

con todo rigor se trata de un nuevo ataque al autogobierno de la comunidad autónoma de euskadi en este caso contra la competencia exclusiva en materia de vivienda

el gobierno continuará defendiendo la integridad del texto la integridad del texto así como la necesidad de que los artículos que en su caso se hayan recurrido desplieguen todos sus efectos sin ninguna limitación etxebizitza legea bere

a esta ley y que la hemos hecho nuestra saben perfectamente que precisamente por correr algunas cuestiones quedaron no debidamente sustanciadas y

posteriormente se vendrá a decir que cumplamos con el espíritu de la ley y no con la letra de la ley y aunque no sé mucho latín
del código civil voluntas legis voluntas legislatoris lo que dice la ley y lo que el legislador quiso decir eskerrik asko

consejeros señorías buenos días la crisis económica entre otras cosas redujo las vías de financiación a las que podían acceder los agentes económicos de euskadi la incertidumbre de hoy aconseja mantener vigente un programa de apoyo a la financiación de circulante a pymes personas empresarias individuales y profesionales autónomas

sabe consejero que este apoyo a quienes son los principales creadores de empleo ha sido un empeño de los socialistas que hemos instado partidas presupuestarias para mantener el estimulo y el impulso

mi grupo se ha venido interesando por la ejecución del desarrollo de este programa y los resultados de su departamento al menos los que nos ha proporcionado

porque nos han parecido escasos en dos mil quince solo se acogieron al programa de apoyo financiero ochenta y cinco pymes apenas la cuarta parte de lo que venía siendo la media anual y si nos referimos a la línea de financiación con garantía pública hemos pasado una media anual de ciento sesenta

y los datos son suyos señor consejero y a los socialistas nos parece que son suficientemente explícitos y preocupantes para que desde el gobierno vasco se planteen acciones y modificaciones sustanciales

para incrementar el interés en este programa para quiénes está dirigido
y quienes realmente apuestan por el futuro del país por crear tejido productivo y por el empleo gracias eskerrik asko

que hay un cambio en los mercados financieros importantísimo

europea eso ha dotado de gran liquidez a las entidades financieras y por lo tanto el problema de financiación

ha desaparecido por un cambio radical en la política monetaria de la unión europea dos desde el lado de la oferta ha ocurrido que ha habido una reestructuración

muy importante y eso ha originado un efecto y es

en los niveles de solvencia de las mismas desde el lado de la demanda esan dizudan bezala atzeralditik atera gara

de celebraciones que queda mucho por hacer y es verdad porque algo está fallando en la gestión del gobierno y de esto no se ha hablado estos días de celebraciones pero es verdad que

porque cómo es posible que solo nueve pymes nuevas y una sola persona nueva se acogiera en dos mil quince a este programa de apoyo financiero es verdad las cosas han podido cambiar han podido mejorar en lo que es el escenario económico y macroeconómico pero no debemos olvidar que si el programa existe es porque hay problema

de esa pequeñas y medianas empresas y de personas empresarias individuales autónomas

lo que habrá que hacer es realmente una reflexión sobre el sistema y si ese programa cómo adecuarlo a las nuevas circunstancias que se puedan estar dando

para el dos mil dieciséis se abrió a una participación pública a una participación ciudadana me da la impresión de que lo que le ha faltado al gobierno es evaluación

para que se ajuste y esas empresas que seguramente estarán dudando ante un escenario todavía hoy de incertidumbre lamentablemente planteándose si crear si salir al mercado

al mundo económico me da la impresión de que no le estamos asegurando con este programa ninguna línea

que tomen medidas que después de aquella reflexión de aquella participación ciudadana el gobierno evalúe y haga un programa adecuado

que acaba de encontrar el gobierno vasco para plantearnos nuevos planes o nuevos programas háganlo ya porque seguramente

eskerrik asko mahaiburu andrea eguerdi on denoi señor consejero hoy venimos a interpelarle sobre la legalidad y la calidad de la prestación sanitaria que se ofrece

cuando acuden a los servicios de urgencias extra hospitalarios es decir a los pac

por el hecho de que ustedes dicen que su política está centrada en las personas

y que vamos a ver cómo se efectúa esta política centrada en las personas en el ámbito de la salud usted y los responsables de la prestación de servicios sanitarios de la osi

de tal manera que la primera atención sanitaria no digo la administrativa que esa es correcta la primera atención sanitaria la efectúen auxiliares administrativos y celadores esa prestación que es términos técnicos se denomina triaje el triaje

es valorado a su llegada a un servicio de urgencias para determinar la urgencia del problema que trae y asignar entonces el recurso adecuado para el cuidado del problema identificado la realización del triaje

tiene muchas ventajas tanto para los pacientes y sus familias como para la organización esta función de triaje evidentemente aquí

la realiza personal sanitario es una función sanitaria médicos y enfermeras son los adecuados para realizar esta función de triaje

para el trabajo realizado y los resultados obtenidos en términos de satisfacción de los profesionales actuantes y los pacientes pero vamos a ver si auxiliares administrativos y celadores son profesiones sanitarias y hemos recurrido a la ley de profesiones sanitarias y la última modificación y el texto consolidado

define la profesión sanitaria como aquellas profesiones tituladas y reguladas cuya formación va dirigida específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de conocimientos habilidades

de acuerdo con esta ley se estructuran en varios niveles nivel de licenciado por ejemplo médicos farmacéuticos nivel diplomado

etcétera nivel de formación profesional están los técnicos superiores de formación profesional como son

y luego están los técnicos de grado medio como son los auxiliares de enfermería y de farmacia aquí revisando esta estructura no aparecen como profesión sanitaria ni celadores ni auxiliares administrativos supongo que coincide conmigo señor

tenemos la duda de si hubiera algún tipo de equivalencia ante estas profesiones

con otras profesiones dentro del sistema nacional de salud dentro de los profesionales estatutarios nos hemos encontrado que dentro del grupo ce dos grupo auxiliar de la función administrativa son equiparados los auxiliares administrativos con taquígrafos

y los celadores dentro del grupo de personal de gestión y agrupaciones profesionales el celador es equiparado a personal de servicios varios mantenimiento

aquí tampoco vemos ninguna equiparación con una profesión sanitaria supongo que nuevamente coincide conmigo para mayor abundamiento hemos examinado los requisitos necesarios para acceder a estas categorías de auxiliar administrativo y celador

y tampoco hemos encontrado ninguna exigencia académica ni formativa ni de titulación sanitaria para acceder a estas titulaciones

mediante de un curso de dos horas dirigido según dicen

de los conocimientos necesarios para la implantación correcta del proceso integrador impartido este cursillo

por el responsable del servicio de urgencias y la responsable de la unidad de calidad

no formado no sanitario como si fuera perteneciente a una profesión sanitaria titulada tal como se recoge en la ley y es que

en los servicios de urgencia hospitalaria el triaje que ya hemos dicho que es

y valorar el tipo de problema que presenta para decidir

si corresponde una atención por enfermería etcétera

estamos tratando de datos especialmente protegidos por la ley la ley de protección de datos ley orgánica ley quince del año mil novecientos noventa y nueve

en datos especialmente protegidos que los datos de carácter personal sobre todo los que hacen referencia a la salud solo podrán ser recabados

expresamente evidentemente como usted coincide conmigo este consentimiento tiene que ser consentimiento informado y no creo que les digan a los celadores

y voy a decidir qué nivel de enfermedad de gravedad presenta usted en este caso se está engañando al ciudadano al paciente se le está engañando porque cuando acude a un servicio sanitario de osakidetza entiende que desde el punto de vista sanitario

sanitario con la garantía de la autoridad sanitaria

autoridad sanitaria para garantizar que los servicios que se prestan a la ciudadanía son por personal titulado y que este personal tiene

bien atendiéndolo directamente bien dirigiéndolo a otro servicio así que dígame usted política centrada en las personas

política centrada en las personas entonces cómo va a resolver usted la asistencia sanitaria urgente en los servicios de atención urgente extra hospitalaria

barrualde galdakao naturalmente respetando la ley y los derechos de los ciudadanos eskerrik asko roncal andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

me interpela usted por un documento entiendo de la osi barrualde galdakao titulado

para uso del personal administrativo y personal no sanitario de los puntos de atención continuada de la osi barrualde galdakao un documento como usted conocerá tanto que me habla de la ley

en el ejercicio de su autonomía de gestión reconocida por la ley de ordenación sanitaria de euskadi y que gracias a su interpelación

entender la justificación y me ha costado entenderle a usted hoy aquí pero bueno luego si eso por lo particular me lo explica en la justificación de la iniciativa

afirma que en el documento se encomienda al personal no sanitario la realización de tareas

la gravedad del caso o diagnosticar el problema presentado por el paciente en consecuencia lo que parece que motiva esta interpelación

la realización de tareas estrictamente sanitarias a personal no especializado ni habilitado legalmente por ello testuaz egin duzun

lo que no sé es qué interés podría tener el departamento de salud u osakidetza en hacer tal cosa

no lo tenemos y además estoy seguro que usted lo conoce pueden estar tranquilas sus señorías porque lo que la señora roncal ha podido entender como una posible e inadecuada encomienda

a personal no sanitario no es más que el resultado de un trabajo realizado en la osi barrualde galdakao para detectar

en los puntos de atención continuada con el objetivo de unificar criterios y evitar ineficiencias un documento impulsado y liderado por los propios profesionales sanitarios apoyado por la dirección de la osi y con participación de profesionales de todas las categorías lo que se ha hecho ha sido trabajar en el diseño

al usuario y usuaria que demanda atención urgente en los llamados pac proceso integrado

del servicio y como todo mecanismo de mejora

este proceso ha pasado a formar parte del programa de formación dos mil dieciséis

con el fin de formar al personal celador de los pac de la

a los profesionales de categoría celador de la lista de trabajo que cubren

bajas o incrementos de actividad proceso en el que el árbol de decisión que parece me ha parecido entender que es lo que le preocupa

la gestión del transporte sanitario notificación de incidencias derivación a otros servicios gestión de incidencias internas etcétera en definitiva un proceso habitual en las organizaciones de osakidetza la calidad del servicio en el que como le he dicho han tomado parte el noventa y siete por ciento de los y las profesionales implicados además han aportado sugerencias que solo pueden surgir de quienes están prestando el servicio

del rechazo que ha podido suscitar la iniciativa y de la verdadera necesidad u oportunidad de la cuestión por la que me ha preguntado inplikatutako profesionalen

horretan atera kontuak kontra daudenak zenbat diren por otro lado y aunque parezca innecesario tener que aclararlo esté usted segura de que en osakidetza las tareas sanitarias las realiza

esta legislatura la anterior y la anterior de la anterior eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna roncal andrea zurea da hitza

organización integrada procesos integrados todo eso que pueda redundar en mejora de la capacitación del personal y en mejorar la atención sanitaria

pero luego eso no sirve para que hagan tareas sanitarias

porque mire ese árbol de decisión verdad por favor cursillo de dos horas me parece muy bien actuación del celador si viene con la boca torcida ha tenido un ictus cómo se puede decir eso cómo se puede poner por escrito incluso para que le celador sepa orientar

porque viene con esta situación que no le podemos atender en el pac no es posible eso no me preocupa que usted mejore

y aplaudiremos todas las acciones que hagan para mejora de la gestión de las tareas administrativas de los transportes

ciudadanos de reconocer si tienen derecho a la atención o no

dónde viven dónde está la ambulancia más cercana todo eso que va a mejorar las circunstancias de la atención sanitaria nos parece muy bien pero la atención sanitaria la tiene que prestar un sanitario y vuelvo a lo mismo usted me dice

personal sanitario pues mire el interés está claro este parlamento le voy a poner un ejemplo solo

de una segunda enfermera en el turno en todos los turnos del pac

de durango estamos esperando que la ponga sabe usted qué le pasa que le falta personal sanitario

interés en no atender a la población con personal sanitario

y por eso utiliza personal no sanitario para realizar funciones sanitarias es lo que queremos decirle que no nos parece correcto que no vamos a aceptar y que cuando usted dice pertsona helburu realmente se preocupe de

los derechos de los ciudadanos y ofrecerles un servicio legal y de calidad nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

señora roncal no creí que a estas alturas iba a volver usted al pac de durango

y actúa como representante popular o actúa como agente sindical pero bueno cada uno hace lo que puede mire a mí no me falta personal sanitario y desde luego no me falta en el pac de landako donde tengo exactamente el mismo personal

que la legislatura anterior yo tengo personal suficiente lo que le hacen falta a usted son ideas suficientes para traer novedades que aporten algo al conjunto

mire en el año dos mil trece y con el objeto trabajar de una manera conjunta y consensuada en lo referente a la atención urgente en la comarca barrualde galdakao

se reunieron todos los servicios que trabajaban en los diferentes aspectos del proceso de urgencias constituyendo un grupo de trabajo personal de atención primaria personal de los pac personal de emergencias y personal del sistema de urgencias hospitalario del hospital de galdakao cosa

en este grupo se integraron todas las categorías profesionales que trabajaban en el circuito asistencial conjunto

dar un mayor dinamismo al grupo e incorporar también a la dirección al mismo a efectos

durante ese año se analizaron con las diferentes organizaciones cómo se trabajaba la urgencia detectando puntos críticos y proponiendo un modelo de referencia de funcionamiento y no saque las cosas de contexto buscando lenguaje coloquial de un profesional hablando con otro de que si no se qué tuerce

este modelo recoge aspectos como la gestión

los pacientes los grupos de interés la cartera de servicios del pac los requisitos legales las competencias específicas del personal el equipamiento crítico etcétera como observará se trata de un trabajo muy alejado de cualquier atisbo de frivolidad

participantes el árbol de decisión que junto con otra documentación como la ficha del proceso y el plan de acciones

para su aprobación como dicta la prudencia antes de decidir

se pilotó y se usó en uno de los pac de manera de que entre los meses de marzo y junio se utilizó como herramienta para facilitar el trabajo

zerbitzuan egunez egun lanean ari diren pertsonek diote después de ese mes de junio se presentó en todas las unidades de atención primaria de la comarca con vistas a realizar una implantación progresiva en sus pac

en el último trimestre del año pasado sin haber tenido a fecha de hoy constancia de ningún problema y mi primer interés ha sido por su interpelación tal y como he comentado antes entendiendo que el tema requería formación previa

se organizó en la comarca y para todos los celadores de los pac

todos los temas relevantes identificación de pacientes notificación de incidencias etcétera asistiendo el noventa y siete por ciento de los trabajadores puede que a usted le parezca poco dos horas ojalá yo cada vez que haga un cambio en osakidetza tuviéramos dos horas retribuidas

para todo el personal porque como usted sabe no es fácil en una organización de nuestro tamaño y dentro de la administración pública

este proceso con su árbol de decisión recoge como competencias específicas las descritas en el decreto de puestos funcionales de osakidetza la ley esa que usted ha nombrado antes

recepción de usuarios traslado de usuarios árbol de decisiones asignación de cita petición de ambulancia facilitación de los trámites de derivación por tanto

que ayude a desempeñar mejor su labor estamos muy lejos de la simplificación

la realización de tareas estrictamente sanitarias y el objetivo del árbol de decisión y el del gobierno es
helburu ojalá usted se sume eskerrik asko darpón jauna

acusaciones de corrupción que sin justificación alguna se han vertido y se siguen vertiendo beraz lehen urkullu jaunak emandako erantzuna gezurra da

lo aprobado por la comisión de investigación sobre respecto al voto a la enmienda

con respecto al auto ha quedado clara esta mañana no hay ninguna novedad el gobierno que está en su tercer año no se ha retirado

en el momento en el que se produzca de todas formas además

habrá que tener en cuenta que el proceso que se acaba de reactivar el auto dictado el tres de marzo del dos mil dieciséis

por las personas acusadas tal y como recoge un medio de comunicación ya una vez resuelto el recurso y siempre que la audiencia confirme el auto cosa que no ha ocurrido

la formulación escrita de acusación algo que tampoco ha ocurrido con posterioridad procederá la acusación por parte de este gobierno que como han oído esta mañana nunca se ha retirado y si el proceso

y el juez dicta el auto de apertura del juicio oral nos personaremos como ya se ha dicho eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

mucho o poco personal le admito que me diga que si privatizamos más o menos cuando es de sobra conocido

y lo queopinan todos los agentes externos lo que no me parece admisible es que cuestione usted ni la transparencia ni la honestidad en la gestión que desarrollamos perdóneme en

por la comisión que no hay que confundir con el voto particular de modificación que no fue aprobado por el parlamento bien pues respecto al cumplimiento de las recomendaciones aprobadas por la comisión le diré que las listas de espera de osakidetza se gestionan directamente

por los servicios sanitarios públicos por ningún agente externo toda la contratación administrativa

del sector público tanto desde la contratación en general como respecto

de las empresas licitadoras y finalmente para la tercera recomendación respecto a las compatibilidades señorías hay un proyecto de ley de empleo público vasco presentado en esta cámara

la interpelación la proposición no de ley que estime oportuno pero las recomendaciones se están cumpliendo

decía recientemente la viceconsejera de turismo del gobierno vasco que uno de cada cinco turistas

por su oferta gastronómica y no solo por los restaurantes se refería también a las empresas vinculadas

usted señora consejera restaurantes en esta zona

hay muchos hablando desde aginaga orio zarautz

sino a los de aquí también empresas relacionadas con la pesca también precisamente será

sobre todo en las conserveras sin olvidar orio zumaia y getaria

del museo del chocolate y está precisamente en mendaro allá donde acaba la gau trena después de deba porque precisamente de bilbao llega a deba pero de donosti no se puede llegar luego

tipo de razones para visitar como por ejemplo es el museo balenciaga que están en getaria también

y acontecimientos deportivos y culturales infinidad tenemos desde las regatas hasta la pelota

zarautz getaria y no olvidemos que este año estamos

lo cual el flujo de usuarios del tren en general

hablamos también de puertos deportivos hablamos de playas no voy hablar

y tampoco tenemos que olvidar bilbo debako tramoak

proposamena hau izan zen el parlamento vasco insta al gobierno vasco

de transporte público a la demanda existente estudie en el menor plazo de tiempo posible y de forma coordinada con la autoridad del transporte de gipuzkoa

bajo deba para atender a los eventos deportivos y socio culturales

en lo que respecta a euskotren es el comité de oferta quien analiza la conveniencia de los

este comité de oferta como usted bien conoce está compuesto por técnicos de euskotren que además planifica el servicio atendiendo a la demanda a la experiencia

además de tener en cuenta la demanda real a la hora de establecer los servicios también se tienen en cuenta los beneficios sociales de los mismos junto con el análisis de la demanda del corredor global de urola kosta

realiza también una estimación coste ingreso demanda de la alternativa del servicio ferroviario nocturno de sábados noches

las hipótesis del servicio eran todos los sábados del año

y año nuevo servicio cada dos horas en ambos sentidos

un material circulando en este análisis se calcula igualmente la demanda que podría tener este servicio nocturno utilizando una proporción real existente en la línea del topo así se utiliza la relación entre la noche de un sábado de fiestas de donostia

y la noche de un sábado normal estableciendo una analogía entre un servicio real de fiestas de donostia y al hipotética demanda de un sábado a la noche en servicio en el posible

con todo ello obtenemos un índice de ocupación del catorce coma treinta por ciento en cuanto al número de personas usuarias estimadas ascendería a sesenta y cuatro por tren lo cual significa unos ciento veintiocho viajes en toda la noche si tenemos en cuenta que puede haber un trasvase

al servicio de costa podríamos estar hablando que tendríamos unos diecisiete viajeros o viajeras más unos treinta y cuatro viajes más lo cual nos daría un total de ciento sesenta y dos viajes todo ello

y teniendo en cuenta toda la noche del análisis de costes se desprende que obtendríamos un índice de cobertura inferior al diez por ciento la media le recuerdo que la media del modo ferroviario en euskotren es del orden del cuarenta por ciento

ha sido elaborada por el comité de oferta de euskotren compuesto por técnicos expertos en operación ferroviaria se entiende que la implementación de este servicio

la demanda a la oferta ni tampoco tendría justificación en términos de rentabilidad socioeconómica eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

el tono utilizado en su respuesta porque hoy por lo visto yo estoy muy sorprendido por algunas respuestas que he oído a otros compañeros a otros parlamentarios

a una compañera de si ha sido elegido por los ciudadanos hasta decirle a otra compañera parlamentaria que se ha confundido pues yo

de su respuesta pero bueno ez naiz

quiero destacar también que la renovación de las concesiones de carretera del territorio histórico la diputación foral de gipuzkoa no incluyó los servicios propuestos por euskotren

los cuales entendemos habían tenido en cuenta la demanda esperada a la hora de planificar los servicios únicamente ha resuelto que la línea u ka nueve zumaia donostia

y la demanda real queda en general cubierta con un solo autobús

por otra parte ni la autoridad del transporte de gipuzkoa ni la diputación general de gipuzkoa nos han trasladado en ningún momento la necesidad de esos servicios en cualquier caso está ofreciendo numerosos servicios para responder a los eventos especiales que suponen una asistencia masiva partidos de la real sociedad en anoeta partidos del eibar

conciertos así euskotren en el año dos mil quince

en más de ciento treinta y cuatro días que corresponden a más de un tercio de los días del año y ha reforzado tanto los servicios regulares diurnos

así como poniendo a disposición de las personas usuarias servicios especiales nocturnos en días especiales en días que no había previsto servicio

en gipuzkoa han sido más de cincuenta días destacando los servicios compartidos en anoeta ipurua

euskal jaiak de zarautz y los correspondientes a urola kosta los servicios correspondientes a urola kosta han treinta sido servicios especiales

gracias señora presidenta señora consejera nunca es tarde si la dicha es buena o más vale tarde que nunca o podríamos seguir

señora consejera que por fin se dan pasos para ampliar el tranvía en vitoria este miércoles se publicaba la información pública del estudio informativo de la ampliación sur del tranvía la primera fase señora consejera usted pedía

urgencia para iniciar las obras ya a alguna administración y yo le pregunto señora consejera qué plazos y actuaciones maneja la señora consejera para iniciar las obras qué administraciones participan y cómo de qué presupuesto estamos hablando y qué cantidad corresponde a cada administración

en esta materia le diré que ahora son pasos más visibles en tanto que tenemos en el boletín

el estudio informativo del tranvía a la universidad eso quiere decir que llevamos detrás mucho trabajo

por tanto efectivamente tenemos el tranvía ampliación a la universidad el estudio informativo

en información pública y también estamos avanzando con la redacción de los proyectos de construcción que deberán de incorporar todo aquello que venga de los estudios

de las alegaciones o de las propuestas que nos lleguen del estudio informativo que está en este momento en exposición pública durante treinta días hábiles

usted por nuestras intenciones pues nuestra intención es seguir dando pasos efectivamente tenemos consignación presupuestaria suficiente como para abordar la parte que nos corresponde

y lo que venimos proponiendo y lo que venimos demandando del ayuntamiento de vitoria en particular bueno del resto de instituciones

con el modelo que hemos seguido en la construcción del tranvía de vitoria en ocasiones anteriores esto es sesenta y cinco por ciento el gobierno vasco y treinta y cinco por ciento las administraciones locales ayuntamiento de

foral de álava estamos trabajando en ese convenio y

después del estudio informativo como decía el proyecto constructivo y siguiente licitación antes de llegar a esa licitación tenemos que tener cerrado el convenio de financiación esos son los pasos que por

señora consejera habla de trabajo previo lo que hemos visto y de lo que tenemos constancia es de toda una legislatura mareando la perdiz con el trasporte y la movilidad en vitoria y toda una legislatura en blanco de la mesa de trabajo de movilidad surge la posibilidad de un convenio para estudiar la ampliación del tranvía al campus a salburua

solución última milla luego insisten en que hay que hacer un estudio urgente para el brt luego en su día

la ingeniería elaboró el estudio y hablaba de dos fases o de todo un trayecto que era hasta

luego acuerdan estudiar el ramal de salburua porque este estudio

no era viable luego en dos mil quince se redacta por el ayuntamiento el convenio para el estudio del brt más

y ayuntamiento convenio que se redacta pero que el gobierno vasco no firma señora consejera por qué no ha firmado usted este convenio que redactó el ayuntamiento por qué no lo ha firmado

como le decía usted no ha firmado este convenio y entonces en aras de qué hago

la primera fase de aquel estudio que hizo la ingeniería y lo saca a publicidad

verdad por lo tanto señora consejera esto sí quees improvisar

esto sí que es hablar del transporte y no hacer nada sí

publicidad propaganda pero es que no hacemos nada más

de vitoria a que se ponga de acuerdo sabe usted dónde están las piedras en el ayuntamiento de vitoria porque el pnv eligió un mal

un gobierno para la ciudad de vitoria en la que vitoria pierde y pierden los vitorianos y usted

porque es un gobierno hipotecado entonces señora consejera no

vías de propaganda electoral cuando sabe que no son viables

encalla en el ayuntamiento de vitoria por eso hace usted esa urgencia al ayuntamiento de vitoria pero sabe que no va a ser posible

desde nuestro grupo estamos en disposición pero es que ustedes han elegido un mal gobierno para vitoria

es usted competente para hacer el brt eskerrik asko lópez de ocariz anderea oregi anderea zurea da hitza

ya lo siento porque trabajamos mucho

en resolver y en mejorar los problemas en este caso de la movilidad de nuestro territorio y ayudar a los ayuntamientos también en la resolución de la movilidad de las ciudades combinadas con el territorio y usted lo sabe usted sabe que trabajamos en eso y que trabajamos mucho y que trabajamos desde hace mucho tiempo

viendo cosas como hemos venido viendo durante los últimos tres años que vamos haciendo en esta materia

en los medios de comunicación evidentemente no sé si tenemos un mal gobierno o un buen gobierno municipal pero lo que sí tengo muy claro es que

está puesta en marcha con el alcalde javier maroto hace más de tres años

no conseguimos llegar a un acuerdo de financiación tampoco con el alcalde javier maroto desde que tenemos el nuevo gobierno municipal hemos seguido dando pasos y en este momento estamos como le decía antes

proyecto siguiente paso licitación por eso insisto en que lo que nos queda por cerrar es la financiación que por la parte del gobierno está garantizada

en cualquier caso estoy contenta porque vengo leyendo y oyendo hoy en los diferentes medios de comunicación que el señor maroto de su grupo